señora presidenta bien este tema yo creo que va a traer menos

que el anterior fundamentalmente porque hemos llegado a un acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista a una enmienda de transacción y desde aquí y antes de nada

su disposición al acuerdo y esta proposición que hoy traemos aquí no es una proposición nueva parte de una iniciativa

presentó y que después fue presentada como proposición no de ley en el congreso de los diputados donde fue aprobada por unanimidad pero si la traemos

con la disposición transitoria segunda del estatuto de gernika y en base al acuerdo alcanzado

la siniestralidad en la carretera es un mal endémico que sufrimos desde hace décadas las cifras de accidentes mortales siguen siendo excesivas aunque también es cierto y es de justicia de reconocer que los últimos tiempos han disminuido

de los cinco mil accidentes mortales que se produjeron en el año mil novecientos noventa y dos en el conjunto de españa

reduciendo en un doce por ciento las cifras del dos mil once

no en vano durante el ejercicio anterior cincuenta y nueve personas perdieron la vida a lo largo de nuestra geografía y a todo ello hemos de sumarle un gran número

por tanto teníamos queríamos realizar esta pequeña introducción para centrar el debate e insistir y reiterar la necesidad de darnos cuenta de la trascendencia de la seguridad vial y de ser conscientes de que estamos ante un problema

la seguridad vial debe ser una prioridad para cualquier gobierno y son necesarias todo tipo de iniciativas y medidas que profundicen en la reducción de los accidentes de tráfico

de que asumimos con cierta normalidad los trágicos balances anuales en torno

y entiendo que debemos realizar de forma continuada un esfuerzo para evitar caer en la resignación

porque detrás de las estadísticas que publican los organismos oficiales existen personas y existen familias que de forma trágica y súbitas se quedan en el camino y ante esta realidad debemos concienciarnos para después revelarnos para evitar que la carretera se siga cobrando vidas

es preciso tener una perspectiva global e integral en materia de seguridad vial y tener en cuenta todos los factores que ayuden los siempre altos niveles de accidentalidad que siempre que sufren perdón nuestras carreteras y la educación vial se antoja fundamental la concienciación de los conductores la concienciación del conjunto de la ciudadanía de la necesidad de realizar una conducción responsable

de la realidad existente y de las consecuencias propias y ajenas

hoy mismo conocíamos que casi la mitad de los accidentes se producen por

debemos realizar campañas institucionales para sensibilizar que alcohol drogas y velocidad excesiva suponen una combinación

debemos insistir en que solo se debe conducir si estamos en buenas condiciones

todos de que un vehículo descontrolado supone una amenaza mortal en muchísimos más casos de los que realmente desearíamos también es necesario mejorar nuestras carreteras el ministerio de fomento anunciaba esta misma semana que iba a destinar buena parte de su presupuesto

y hay que tener en cuenta que una de las principales causas de los accidentes de tráfico que se producen en nuestro país además de agravar la severidad y magnitud

alrededor del cuarenta por ciento de las víctimas mortales y heridos con secuelas graves se producen por la combinación de exceso de velocidad unido al exceso de alcohol

esa velocidad y además de concienciar a los conductores deben adoptarse otras medidas y una de estas medidas para mejorar esa seguridad a la hora de transitar por nuestras vías tanto urbanas como interurbanas es la colocación de radares que tengan efectos disuasorios sobre los conductores

son muchas las denuncias ciudadanas que protestan porque los radares no se encuentran fijados en aquellos lugares donde se produce una alta concentración de accidentes

en otros como décimos en la iniciativa con el objetivo de intentar cazar al conductor para que pague la multa son por ello muchas las voces que se alzan diciendo que una gran mayoría de los radares se encuentran posicionados en lugares en los que más que estar dirigidos a la prevención

y cuando estamos hablando de vidas humanas cuando hablamos de secuelas irreversibles no podemos anteponer el aumento recaudatorio al efecto disuasorio y preventivo los radares deben por ello ser colocados en lugares que permitan cumplir con su función que no es otra como décimos que disuadir a los conductores y conseguir una conducción acompasada a los limites de velocidad establecidos en cada tramo y por ello lo deseable es que se coloquen en aquellos

previamente su existencia con el fin de reducir dicha velocidad aunque como decía la realidad en muchas ocasiones es bien distinta y son numerosos los radares que están colocados con el objetivo de recaudar y engordar las arcas públicas y entendemos y se ha dicho esta mañana hoy aquí viviendo en una coyuntura de dificultades económicas pero los poderes públicos debemos aunar esfuerzos para reducir la mortalidad en las carreteras aunque ello no conlleve incremento recaudatorios porque el radar

la función que debe cumplir es con esa función preventiva y por ello ser colocados en aquellos lugares que no tengan previsto recaudar dinero sino recaudar vidas humanas su labor preventiva colocando en puntos negros

absolutamente demostrado los datos no engañan y una colocación adecuada de los mismos ha producido una reducción del cincuenta y dos por ciento de los indicadores de siniestralidad en aquellos puntos en los que se realizó su colocación con la clara finalidad de que los conductores moderasen su velocidad

vasco en el ámbito de sus competencias utilice la herramienta de los radares para que los conductores reduzcan la velocidad y para que se pueda disminuir la siniestralidad en las carreteras vascas en la comunidad autónoma tenemos alrededor de setenta radares fijados en nuestras vías como décimos

donde los índices de accidentalidad son inferiores a la media la media española es de seis coma diecinueve radares por cada mil kilómetros en euskadi tenemos

por cada mil kilómetros y de los veinticinco radares que más multan en españa cuatro están en euskadi por poner un ejemplo de esta multitud de radares que los vizcaínos conocemos bien en los túneles de malmasín tenemos

tres en un sentido y tres en otro creemos que con uno en cada sentido para la moderación de la velocidad sería suficiente y los otros cuatro pueden ser recolocados en otros lugares existe un estudio del observatorio de la seguridad vial que apunta que los radares fijos funcionan fundamentalmente en carreteras con velocidades medias o altas pero que en carreteras con menor velocidad o semáforos su eficacia no es tanto por ello

siguiendo criterios preventivos y no recaudatorios en ese sentido la enmienda que nos había presentado el grupo socialista nos parecía adecuada y finalmente parte de esa enmienda parece recogida en la enmienda de transacción en la que se

en esta red viaria vasca incluyendo un diagnostico para la ubicación de radares una vez contratado los datos de siniestralidad como decía al principio

la mejora de los viales también las campañas institucionales igualmente pero quien más puede hacer por evitar accidentes y salvar vidas somos todos y cada uno de los ciudadanos realizando una conducción cívica racional y sobre todo prudente

porque ellas el mejor aliado del conductor y el mayor enemigo de la siniestralidad la reducción de los accidentes debe ser

no podemos permitirnos que los accidentes en carretera sigan siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país y no podemos permitirnos el lujo de tratar a los accidentes como mero registro estadístico en la reducción de la siniestralidad requiere un enfoque global

y la acción propuesta en esta iniciativa aunque es una acción individual

de medidas que deben confluir para esta reducción la propuesta de colocación en esos puntos de concentración de accidentes a buen seguro ayudará y provocará un efecto disuasorio entre un buen número de conductores y por lo tanto pondrá su granito de arena en este objetivo común a la que toda la sociedad aspiramos porque

bien uno de los costes más trágicos que tenemos que pagar por haber construido esta sociedad moderna y motorizada también un tanto agitada y alterada

sus víctimas quiero aprovechar la oportunidad que nos da la proposición no de ley presentada por el grupo populares vascos para recordar a todas las víctimas de accidentes de tráfico

es un dato objetivo que las víctimas mortales por accidente de tráfico disminuyendo tanto en el estado español como en euskadi pero nunca podremos hablar de datos positivos mientras se sigan produciendo víctimas mortales en la carretera en españa entre dos mil siete y dos mil doce las víctimas mortales por accidentes de tráfico se redujeron más de la mitad

en euskadi en dos mil once se produjeron en las calles y carreteras vascas

con el resultado de sesenta personas fallecidas en el acto o antes de transcurridas las primeras veinticuatro horas esto nos sitúa en ratios similares a los de los países más avanzados en esta materia como son reino unido suecia o los países bajos pero como he dicho antes no podemos mostrarnos satisfechos en esta cuestión por lo que es una obligación de todas las administraciones públicas

son muchas las medidas que se pueden tomar para evitar la violencia vial y sus efectos empezando por la concienciación siguiendo por la prevención y también por qué no

todas ellas en cualquier caso deben ir dirigidas a la consecución

del objetivo común del mismo objetivo la causa más importante de agravación de los accidentes de tráfico es decir la provocación de vidas mortales es el exceso de velocidad por lo tanto se deben adoptar medidas

a sobrepasar los límites de circulación la primera condición que habrá de cumplirse para evitar accidentes

en este caso la concienciación la prevención o incluso las medidas disuasorias son herramientas importantes para la consecución del objetivo

es una herramienta adecuada que debe tener un carácter preventivo y también disuasorio para evitar el exceso de velocidad por lo tanto

la ubicación de los radares fijos debería realizarse en ellos

no con afán recaudatorio sino para prevenir accidentes hay que

y con la suficiente visibilidad somos conocedores de que la red viaria vasca rápida tiene una cobertura importante de radares fijos que en el mayor número de casos siguen los criterios comentados por eso

se cifra en la red secundaria por ello como se ha comentado anteriormente hemos propuesto que se inste al gobierno vasco a realizar estudios específicos en toda la red viaria vasca incluyendo la secundaria para

como ha dicho la portavoz del grupo populares vascos hemos llegado a un acuerdo con ese grupo y con el grupo nacionalistas vascos para en una enmienda de transacción que recoge las dos cuestiones que se están planteando la ubicación de radares fijos en los puntos de concentración de accidentes o en los puntos negros de mayor siniestralidad y el estudio que permita

secundaria con radares adecuados y que vayan en la línea que hemos comentado de lograr

más prioritariamente los accidentes mortales en carretera muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

aunque no cabe duda de que en muchos casos los radares pueden minorar la accidentabilidad no siempre son la solución por eso son también necesarios los estudios específicos ya que hay otras medidas que se pueden adoptar van desde el propio estado de la red viaria hasta la señalectica en algunos casos serán suficientes por sí mismos y en otros casos deberán ir combinados con los radares en cuanto al acuerdo

en la enmienda de transacción con el resto de las instituciones parece evidente por las distintas competencias de las mismas así la determinación de los tramos de concentración de accidentes

que no son travesías son de competencia municipal también las autopistas tienen sus competencias en cuanto a lo que se ha dicho voy hacer unos breves apuntes que considero necesarios

pintados que se publican en el boletín oficial del país vasco

se ubican según las necesidades en función de los datos de siniestralidad

con respecto a por qué se ponen los radares los radares se colocan en función de los datos reportan los estudios de siniestralidad y con el objetivo de minorar la accidentabilidad el incumplimiento de las normas es lo que determina la sanción

los radares solo denuncian el incumplimiento de las normas los radares no sancionan su objetivo

por exceso de velocidad así pues el objetivo de reducir la siniestralidad es lo que nos guía a todos también en cuanto a la colocación de radares